vamos a reanudar el pleno de acuerdo a la

resoluciones en registro intervendrán primero el grupo mixto después elkarrekin podemos luego bildu a continuación partido popular ciudadanos socialistas vascos y nacionalistas vascos tiene por tanto la palabra el grupo mixto señora martínez

las resoluciones que ha registrado el grupo mixto vox giran en torno a los aspectos fundamentales que he expuesto en mis intervenciones anteriores y que se pueden resumir en

el país es españa españa puede competir y no diecisiete autonomías es preciso fomentar y facilitar la participación de agentes ajenos al gobierno

es necesario realizar cambios legales para hacer posible la financiación de proyectos el gobierno vasco tiene la responsabilidad de velar por la igualdad territorial

municipios barrios todos para luchar contra una pandemia que es global que desde luego no es local

en una disputa entre comunidades autónomas para pillar el mejor trozo del pastel y todos sabemos en qué se traducen esas peleas amiguismo corrupción y pillaje

basado en la solidaridad con aquellos a quienes más ha afectado la crisis con independencia del lugar en el que residan propiciar la máxima participación es decir gestionar un plan a espaldas de la sociedad solo puede dar como resultado

y eso es lo que está haciendo este gobierno los partidos que lo conforman no hay participación que no sea la suya

ni de los sindicatos tampoco de las patronales y menos aún de las empresas a las que esta crisis está poniendo en peligro y seguro que además tienen muchas cosas que decir

pero ahí no debería de acabar la apuesta de este ejecutivo por la participación en vox consideramos que también las universidades tienen mucho que decir en este proceso especialmente a la hora de hacer una evaluación seria e imparcial

adecuar nuestra regulación es otro de los puntos entiendo que ustedes saben que nuestro marco legal no está preparado para ejecutar proyectos en las condiciones que plantea

y esta es una cuestión que requiere la máxima atención en el ámbito de la legislación en vigor en materia de contratación pública sin abordar una modificación de esta será imposible ejecutar inversiones y desarrollar proyectos y urge además analizar fórmulas para la mejora de la eficiencia del sector público para mitigar el deterioro del gasto público y su efecto en el déficit de nuestra comunidad autónoma derivado del gasto extraordinario realizado

en mis anteriores intervenciones ya he señalado que una vez más los partidos del gobierno apuntan maneras

de álava y de gipuzkoa provincias en las que su peso y su presencia son menores es algo que viene de lejos y a lo que no estamos dispuestos a acostumbrarnos es una inexcusable responsabilidad de este ejecutivo garantizar la igualdad territorial que el virus ha demostrado no entender de municipios provincias o comunidades autónomas que la crisis ha acotado a las tres provincias vascas por igual

en euskadi para el turismo y para la hostelería sin embargo todo parece indicar que el gobierno tiene la firme intención de priorizar

dejando un tanto de lado a las miles de personas que en el país vasco viven de la actividad a la que he señalado y además las han tratado como chivo expiatorio de la pandemia

en resumen las resoluciones sometidas a votación por vox persiguen un modelo único de país garantizar la igualdad territorial de proyectos e inversiones concentrar las ayudas en los sectores que más han sufrido la crisis

propiciar la máxima participación y transparencia en el proceso

adecuado para hacer posible la ejecución y financiación del correspondiente plan muchas gracias gracias señora martínez

decir que hoy a la mañana se han dicho aquí ciertas cosas que a nosotros y a nosotras nos han dejado bastante estupefactos

de hecho lo ha dicho el señor consejero que los grupos parlamentarios disponemos de la misma información que el gobierno en relación con lo que corresponde

falso a día de hoy desconocemos con qué colectivos se ha reunido el gobierno vasco para la definición de ese listado que se va a enviar el día veintinueve

empresariales o sociales dónde se han efectuado esas reuniones y a su vez también desconocemos cuáles son los criterios que se han seguido más allá

con los tres ayuntamientos de las capitales vascas qué criterios se han seguido en el caso eudel en consideración a los municipios de este país en su definición del documento de proyectos que será enviado el día veintinueve también

y de colaboración claramente definido en consonancia con lo que aquí se aprobó por parte de los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno vasco y tampoco es cierto no conocemos cuál es el modelo de participación y de colaboración por lo menos en lo que respecta a los partidos aquí representados y que

de la oposición el único momento que hemos tenido de participación real y de capacidad para presentar proyectos ha sido este

del gobierno ni de los partidos que le sustentan sí se ha dicho existió la semana pasada la comisión

diferentes cuestiones entre ellas según parece con quiénes se había reunido el gobierno vasco para la definición de esos criterios y también el cómo

se habían alcanzado esas conclusiones bueno esto es

de las resoluciones que nos ha presentado el pnv y el partido socialista básicamente son pues copia y pega de las directrices que la unión europea ha verbalizado

pero sin ningún tipo de consideración propia o especificación propia con respecto a lo que aquí en euskadi concretamente se va a hacer o se ha hecho o qué criterios se han utilizado esa es básicamente la conclusión que sacamos de las resoluciones que hemos leído de los grupos que sostienen al gobierno

de la comisión que se nos vino a decir lo que ya sabíamos lo que ya sabíamos y lo que es público más allá de eso cuál ha sido el proceso que el gobierno vasco ha seguido hasta llegar a hoy aún a día de hoy lo desconocemos lo único que conocemos y fue algo que se verbalizó por parte de los diferentes grupos de la oposición también en esa comisión

lo único que conocemos es el listado que se presentó en verano de hecho el listado que se presentó en verano es la génesis de este monográfico

no se hubiese hecho ese listado inicial y no nos hubiesemos encontrado meses después con esa filtración

pleno en el que se debatió esa moción seguramente que hoy no estaríamos aquí porque probablemente los partidos que sostienen al gobierno vasco

en ese pleno en el que se aprobó la moción de los partidos que sostienen al gobierno municipal o sea del gobierno vasco perdón que vengo del ámbito municipal y a veces me sale del gobierno vasco

un mecanismo de participación y de colaboración que a día de hoy insisto

no conocemos además por los plazos en los que nos encontramos lo más previsible es que lo que hoy

una virtualidad material es decir no sé los criterios que hoy aquí salgan adelante cómo van a modificar lo que presumiblemente ya estará definido que es el documento que el día veintinueve se va a enviar al gobierno de españa porque desde luego si no hay a día de hoy

pues es casi peor es casi peor no tenerlo a día de hoy hecho no habernos tenido en consideración y por tanto damos por hecho que sí que habrá algo pero lo desconocemos y desde luego de las resoluciones tampoco hemos podido sacar

elkarrekin podemos ezker anitza más allá de las propuestas que ha realizado y que parte de ellas ha transaccionado finalmente con eh bildu en lo que respecta

una vez los fondos hayan llegado y también del proceso previo que hubiese tenido que existir o que debería de existir hemos presentado también es cierto una batería de propuestas

plenamente conscientes de que hubiese sido ideal bueno más bien

un marco utópico hubiese sido lo propio que todas esas propuestas que nosotros hemos presentado

lo hemos tenido que traer aquí hemos tenido que traer aquí esas propuestas materiales y de contenidos porque no ha existido ningún otro foro habilitado para que nosotros pudiesemos proponer esas propuestas de contenidos

agentes empresariales y sociales que sí que han tenido un foro para poder hacer aportaciones a ese documento

insto a que por favor se verbalice cuál ha sido ese foro y quiénes concretamente han podido aportar ese documento y que cuando ese documento se envíe

por el consejo de gobierno que por favor se diga concretamente esos proyectos cuáles son los que vienen pues del ámbito empresarial de los diferentes colectivos imagino que sindicales no habrá entre los proponentes pero que en cualquier caso se especifique de las sesenta y seis resoluciones excluyendo digamos las que han dado de sí la transacción con eh bildu

un sistema diferente de colaboración y de articulación de propuestas comunes en ese

el proyecto que se va a enviar desde el gobierno vasco al gobierno de españa decir que y voy a hacer aquí una breve enumeración consideramos que son importantes

las referidas a la transformación de los servicios públicos de cuidados en euskadi eso lo verbalizamos también en la comisión consideramos que

que este era uno de los ejes que había incorporado el gobierno de españa y que no venían entre los ejes que

incorporaba este eje de trabajo pero no ha sido posible porque no hemos ya digo visos de poder abordar estas resoluciones

una nueva economía de los cuidados y políticas de empleo un pacto por la ciencia la innovación y por el refuerzo del sistema sanitario y por la educación y la formación continua un plan de digitalización de la enseñanza pública en euskadi

muy complicado llegar a acuerdos en relación con esta cuestión que dicho plan abarcara todas las etapas educativas desde los cero a tres años hasta la upv

la facilitación de los medios electrónicos necesarios al conjunto del

a quienes por cuestiones de renta lo estén pasando peor también planteábamos un fondo para la continuidad de las empresas en crisis consensuando y reorientando ciertas actividades a nuevos nichos de mercado tampoco creemos que hubiese sido complicado

si hubiesemos tenido el foro y el espacio para hacerlo planteábamos que se reactivaran zonas degradadas o que a día de hoy sufren

transformar el instituto vasco de finanzas en una banca pública el rescate de la naval y

prohibir la inversión en la exploración y explotación de hidrocarburos que hoy por cierto hemos conocido la noticia de hoy a mañana de que el partido socialista en álava se ha manifestado en contra

y la verdad es que decir que nos congratula la noticia y esperamos que sea el inicio también aquí en el parlamento vasco de acuerdos en relación con materias de este tipo pero esta era una resolución que también planteábamos porcentajes mínimos de inversión en el ámbito

públicamente que también estaban por esa labor un consejo consultivo

de las propuestas del gobierno vasco a los agentes sociales y expertos a posteriori mecanismos de control para monitorizar a los perceptores de las ayudas y comprobar que cumplen las normativas vigentes también

que se incentivara la inversión en lo público es decir

a proyectos que se lideren desde lo público y reducir la capacidad de hacer uso de estos fondos a aquellas empresas que

en bolsa y sería un largo listado pero bueno

con un no en bloque por parte de los grupos que sostienen al gobierno

nos da mucha pena y nos parece que así va a ser difícil construir

de país que permitan generar las bases de recuperación necesarias en euskadi por mi parte

reiterar la idea de que aquí hay básicamente dos planos uno que tiene que ver con los procesos y con los sistemas de control y en ese sentido yo creo que prácticamente los grupos de la oposición o la totalidad de los grupos de la oposición tanto en la comisión de la semana pasada como hoy aquí

que no que no ha sido el cauce adecuado

cuáles han sido ciertas metodologías utilizadas por parte del gobierno vasco para esa definición de proyectos el documento definitivo y luego por otro lado por otro lado está el apartado de los contenidos

no quiero extenderme en todas las resoluciones que hemos presentado en relación con esto estamos convencidos de que otras formaciones tienen

contenidos y propuestas muy interesantes para poder presentar por desgracia

para poder abordar lo que tiene que ver con contenidos prácticos y materiales que se podrían trasladar a ese documento definitivo y en ese sentido decir que nosotros de aquí hasta

abordar ciertos de esos criterios que hemos presentado hoy aquí como propuestas válidas e incorporar en ese documento definitivo que se mande el día veintinueve insistimos seguimos tendiendo la mano para que si no es hoy por lo menos en las próximas semanas exista esa

para poder trasladar ciertas iniciativas a ese documento definitivo y que esto sea un proyecto de todos y de todas porque desde luego lo que va a salir hoy de aquí con votaciones en bloque negativas a propuestas de los partidos de la oposición

o no reflejan nada nuevo en el modo en el que el gobierno vasco o los partidos que le sustentan conciben los acuerdos en esta cámara eskerrik asko

muchas gracias señor soto tiene la palabra por el grupo bildu señor otero

la opción a la oposición de plantear un debate sino que ha sido la oposición la que ha propiciado este intento

desde luego lo que ha quedado claro es que no hay pnv suficiente para el reto que tenemos delante se nos ha criticado por hacer ataques injustificados al gobierno

hablar si quiera un minuto del proceso seguido realmente un proceso en el que aún no sabemos cuál es

eso sí se nos exige un trabajo constructivo yo lo avisé el primer día que hablé de esto si se pide corresponsabilidad se debe ofrecer codecisión

a un plan que no se nos va a enseñar es inaudito lanketa eraikitzailea egin dela esaten zaigu nola jakin

y se decía también que ha habido muchos agentes consultados y se preguntaba retóricamente si se les ha oído quejarse respuesta

sí hay que estar muy sordo para no haber tenido noticias del terremoto que se ha formado con el tema

es un escándalo para el modelo de gobernanza que manejan algunos

aunque roce lo delirante se puede llegar a entender

difamaciones continuadas que se dicen gratuitamente que no son propias realmente ni de comentario de batzoki se le escapan a usted frases como la de si fuera por ustedes estaríamos sin empresa o sea piense un poco en lo que dice se puede ser políticamente todo lo sucio que se quiera

pero lo que no le pasamos es que sea mentirosa y lo ha sido y lo ha sido el viernes

y acordamos que el lunes nos intercambiaríamos las propuestas de resolución el domingo a la noche usted nos dijo que no podía ser que no nos enviaba sus propuestas y que por tanto

y hoy nos ha acusado aquí de no haberle enviado las propuestas con antelación para poder debatir

no pasamos y esto lo tiene que rectificar yo se lo pido no vale todo y el crédito político de cada uno se juega en todos los detalles no vale mentir guk ez dugu asmorik

hemos realizado un ejercicio de emprendizaje político colectivo que busca alejarse de nostalgias de tiempos añorados que no volverán de recuperar

y colapso climático y que como señalábamos incorpora muchos de los componentes que explican el origen de lo que estamos viviendo lehen esan bezala

tiene la palabra el grupo popular ciudadanos señor gordillo

señorías miembros del gobierno señor lehendakari el debate que teníamos

de los proyectos prioritarios para euskadi en el marco de los fondos europeos para la recuperación

con distintos modelos modelos en los que estiman que la selección de los proyectos tiene que ser de tipo dialogante dialogador o se puede buscar otro tipo de palabras entre

hay otras versiones que plantean que los proyectos tienen que seleccionarse de acuerdo con unos procedimientos más o menos negociados nosotros lo que hemos propuesto siempre

y la selección de los proyectos se haga con una metodología que implique siempre la máxima transparencia ese es el elemento principal que nosotros queremos subrayar y de hecho es uno de los fundamentos de o el fundamento principal de las propuestas que nosotros planteamos aquí esta tarde

la situación que tenemos ante nosotros es una situación muy complicada muy compleja no tengo que decirlo a los miembros de esta cámara y lo sabemos todos europa ha sido la vía de salvación de nuestra comunidad de euskadi de españa en muchas ocasiones esta mañana lo hemos dicho

las cuestiones relativas al pacto de estabilidad la crisis financiera

la verdad es que después del debate pues nos seguimos reafirmando en que es muy necesario el compromiso con europa por eso y quiero ser realmente breve porque creo que ya todos los grupos han manifestado su visión nuestras propuestas que son ocho se concentran en torno a tres ejes fundamentales en primer lugar la reivindicación de europa

que tiene que ser lógicamente de control al gobierno y ante el que se dé las explicaciones pertinentes sobre lo que es la gestión de la cosa pública en general y sobre todo sobre esta cuestión tan importante como la relativa a los fondos europeos y luego finalmente en tercer lugar también nuestras propuestas giran en torno a buscar la máxima eficiencia y eficacia de estos fondos y para eso creemos también que es importante el reivindicar un órgano de control un órgano específico de control independiente autónomo

de verdad en la materia de la gestión de políticas públicas que lo controle por eso

habituales que cualquier estado o cualquier administración puede tener sino que en este caso lo que se nos exige es realizar una serie de reformas importantes una serie de reformas que realmente supongan un cambio para la siguiente generación que es la que da nombre a este proyecto por eso nosotros desde nuestro grupo la verdad es que seguimos tendiendo la mano porque creemos que es importante realizar una serie de reformas que son fundamentales sintéticamente

sintetizarlo ahora creemos que los proyectos tienen que ir en una

hay que crear empleo de calidad para la era digital esto es muy importante transformar

en educación aprovechar esa transición ecológica para liderar la economía verde devolver nuestra sanidad a la posición de liderazgo mundial que nunca debió abandonar

eficaz eficiente y sobre todo transparente en ese sentido las propuestas que nosotros hemos registrado en la mesa de la cámara en este hueco que hemos tenido a lo largo de la mañana giran en torno a esta cuestión

y que es la que afortunadamente en virtud de un acuerdo con

a desde la diferencia evidentemente que las tenemos pero por lo menos intentar llegar a quizá un mínimo o un acuerdo mínimo

a que la selección de los proyectos que se haga sea siempre

competitividad y que sea siempre buscando la capacidad de estos proyectos para reactivar la economía crear empleo y garantizando el equilibrio interterritorial

esto sería una buena síntesis de lo que se debe buscar con estos proyectos es por eso que nosotros desde aquí queremos reivindicar

que insisto no es una metodología simplemente de esperar unas transferencias de cara a las comunidades autónomas en españa se enfadan y se pelean o compitan simplemente

lograr los mejores proyectos siempre en un marco de colaboración entre las administraciones entre todas las comunidades autónomas y también con la administración central con la administración del estado esa es la propuesta que nosotros hacemos esas son las propuestas que nosotros hemos

que también colaboramos en el gobierno de europa en la comisión europea en el parlamento europeo y desde ahí es de donde

a que presentara este programa para la reconstrucción de europa después del coronavirus sintetizando mucho también quería

pero vamos en todo caso a mí me ha llamado la atención a lo mejor el listado de propuestas que tenía el grupo elkarrekin podemos

que eran sesenta y tantas propuestas que han presentado

yo creo que más que relativas a lo que debe ser el marco general la metodología de la selección de proyectos eran como cuestiones pues yo qué sé a veces más relacionadas con la política local como ha dicho antes

o cuestiones relativas con situaciones muy concretas pero hombre un proyecto tiene que ser no un parrafito no un párrafo un parrafito no quiero desmerecer en absoluto no solo un párrafo resumido sino hombre

yo creo que lo razonable es que se siga el método normal

cuáles son los requisitos la convocatoria oiga cuáles son los objetivos

eventual cofinanciación etcétera etcétera es que si no hay un proceso y si no hay una metodología de recepción en este caso de proyectos pues hombre pues sí

pues una batería de cien doscientos trescientos propuestas que básicamente pueden ser nuestro programa electoral pero hombre yo creo que

de interpretación mía pero yo creo que de lo que se trataba hoy sobre todo era de sentar un poco las bases de lo que debe ser

por eso yo creo que insisto los tres puntos fundamentales por parte de nuestro grupo que es la reivindicación de europa en segundo lugar es la reivindicación también de este parlamento también como órgano de control es verdad que el gobierno tiene una mayoría muy cómoda pues evidentemente que imagino que le facilita mucho el trabajo parlamentario claro que sí

pero hombre en otros sistemas parlamentarios por ejemplo el británico la presidencia del parlamento suele garantizar iguales tiempos a la oposición que al gobierno a pesar de que el gobierno tenga muchísimos más escaños que la oposición no es un tema una convención británica

donde quizá desde el principio se podría haber contado pues con ella o en cualquier otra comisión una comisión ad hoc específica para

cuestiones presupuestarias y finalmente también

y sobre todo que no se nos olvide que esto no es una transferencia adicional para

proyectos autónomos o proyectos propios de cualquier administración sino que de lo que se trata precisamente es de innovar con proyectos que sean capaz de remover la economía

una serie de cuestiones sobre todo tendentes a recuperar el empleo y mejorar la economía yo creo que aquí ciertamente nos movemos en el marco aunque a alguno no le gusta la palabra pero es que es una economía liberal en el marco de una economía social una economía social de mercado partiendo de unas bases liberales lo que pasa que en este parlamento hay bancadas que cada vez que se pronuncia la palabra liberal pues se les pone un poco los pelos de punta pero vamos quizá porque no no sé tenemos concepciones distintas de lo que quiere decir pero vamos que lo sepan la unión europea defiende un sistema económico basado en la economía social de mercado partiendo de una

en un contexto de una cierta intervención por parte de los poderes públicos pero precisamente destinada a mantener la libre competencia del mercado que esa es la esencia

y simplemente esto el debate de hoy ha yo creo que ha sido un debate que ciertamente a todos nos ha ayudado un poco pero habría estado mejor que hubiéramos hecho quizá este debate antes

es la relativa a que este parlamento celebre otra sesión monográfica cuando tengamos finalmente los proyectos

para su eventual financiación que recuerdo estamos dando por sentado que los proyectos que salgan del gobierno vasco y que salgan del gobierno nacional van a ser automáticamente financiados pero conociendo la metodología de trabajo

es conveniente que quien tenga la responsabilidad de seleccionarlos finalmente lo haga con criterios de la máxima eficiencia de la máxima eficacia y de la máxima capacidad estos proyectos para de verdad

y de verdad que suponga un crecimiento sostenido a largo plazo para nuestra sociedad y esa siguiente generación que es a la que realmente está dirigida toda esta actividad muchas gracias

gracias señor gordillo tiene la palabra el grupo socialistas vascos señora corcuera

el objetivo de este pleno era determinar la orientación estratégica y los proyectos prioritarios de la comunidad autónoma vasca en el marco de los fondos europeos

obedecen a varios criterios primero la alineación de todas las propuestas de resolución presentadas con el programa de gobierno dos mil veinte dos mil veinticuatro

con los ámbitos emblemáticos de la comisión europea con los cuatro ejes y las diez palancas transformadoras del plan de recuperación transformación y resiliencia

en segundo lugar pretendemos encajar la orientación de múltiples proyectos ya estructurados por los departamentos del gobierno vasco las diputaciones forales y los ayuntamientos

pretendemos poner de manifiesto también que el mecanismo de recuperación y resiliencia es el fondo más importante y tiene como objetivo el acometer reformas e inversiones

de la unión aumentando la resiliencia el potencial del crecimiento y la capacidad de adaptación de los estados miembros mitigando el impacto social y económico de la crisis

contribuyendo así en definitiva a la convergencia económica y social y a la creación de empleo hay que tener en cuenta

un cambio estructural y tengan un impacto duradero sobre la resiliencia económica y social

y sobre el empleo el cuarto criterio es que en las resoluciones registradas ponemos de manifiesto que los socialistas vascos apoyaremos también iniciativas y proyectos que encajen

el treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós y que opera como los fondos estructurales pero con mayor flexibilidad y agilidad en la ejecución

es un programa además gestionado en casi un noventa por ciento por las comunidades autónomas en nuestras resoluciones hemos manifestado también el interés de los socialistas vascos en recoger tanto los ejes como los ámbitos de cada eje en los que se basa

el marco de proyección de las diversas iniciativas y estrategias de las instituciones de las entidades de las organizaciones y de las empresas para ser destinatarias de los fondos europeos ponemos también de manifiesto la necesidad de contar en euskadi con un plan de recuperación y resiliencia propio

como contribución al plan de recuperación de transformación y resiliencia del gobierno de españa que se va a presentar a la unión europea

la mayor cuantía de recursos del mecanismo de recuperación y resiliencia

con el fin de impulsar una euskadi que progrese de forma cohesionada y que dé oportunidades a sus jóvenes que dé oportunidad de seguridad en los cuidados a los mayores que preserve la salud y que refuerce la calidad del empleo sin dejar a nadie atrás

dar cobertura a los planteamientos estratégicos expuestos ya por las instituciones y agentes vascos con sus correspondientes actuaciones para el periodo dos mil veintiuno dos mil veintiséis y debe plantear las posibles reformas legislativas y normativas que van a ser necesarias para responder a los requerimientos del mecanismo de recuperación y resiliencia

de ahí que establezcamos que los proyectos o inversiones que se incluyan en ese plan propio deben ser viables deben ser factibles técnicamente mensurables y deben de completarse su ejecución antes de diciembre de dos mil veintiséis estos son los criterios que hemos hecho valer por medio de las resoluciones que hemos registrado

lo que interesa es incidir en el tejido productivo de los estados miembros y por eso proponemos que este plan los proyectos e inversiones que se contengan en él especifiquen qué componentes contribuirán a los siete ámbitos emblemáticos de la unión europea que recomienda además a los estados miembros queremos saber qué componentes se alinean con la puesta en marcha temprana de tecnologías limpias

o con la mejora de la eficiencia energética de los edificios o qué proyectos se corresponden con el fomento de tecnologías limpias para acelerar el uso de un transporte sostenible accesible e inteligente o con el despliegue rápido de servicios de banda ancha rápida en todas las regiones y hogares incluidas las redes de fibra

o con la digitalización de la administración y los servicios públicos o con el aumento de las capacidades industriales en materia de datos en la nube

con la adaptación de los sistemas educativos en apoyo de las competencias digitales y la educación y formación profesional a todas las edades

transformación y resiliencia del gobierno de españa que se basa en cuatro ejes transversales la transición ecológica la transformación digital la cohesión territorial y social

y se estructura en torno a diez políticas tractoras que van a incidir directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación en el tejido económico y social esas diez palancas del plan de españa de recuperación y resiliencia

la cohesión territorial las infraestructuras y ecosistemas resilientes la transición energética justa e inclusiva la administración pública del siglo veintiuno

y de la pequeña y mediana empresa impulso al emprendimiento

la educación y la formación continua desarrollo de capacidades la nueva economía de cuidados y políticas de empleo

y queremos que los proyectos que se incluyan en el plan vasco de recuperación y resiliencia tengan un carácter estratégico para la entidad o institución promotora y que los diversos componentes de las iniciativas vascas sumen y sean coherentes con la estrategia vasca de desarrollo y recuperación

en definitiva pretendemos que las estrategias multisectoriales y que provengan de las instituciones vascas respondan a planes estratégicos de instituciones organizaciones y empresas vascas

del programa de gobierno el eje de la prosperidad el eje de las personas el eje del planeta el eje del autogobierno y también las iniciativas del gobierno vasco que recoge euskadi next

al ser este programa la respuesta institucional vasca para afrontar la crisis económica provocada por la pandemia sanitaria

recursos presupuestarios propios sin considerar inicialmente posibles fondos adicionales europeos

de que es un programa contrastado con la mesa de diálogo social y con los agentes económicos y sociales de la mesa socioeconómica cuyas aportaciones han sido incorporadas

a cuatro años para transformar euskadi para construir una euskadi más verde más digital y más inclusiva en la línea con la estrategia europea

estrategia que sumada a los programas institucionales y proyectos empresariales y de entidades socioeconómicas configuran una hoja de ruta para cuyo primer hito es la presentación de euskadi next el propio veintinueve de diciembre

en dos ejes primeo el eje de las apuestas transformadoras de país en el que se integrarán proyectos estratégicos vascos

que nos permitan posicionarnos y afianzar nuestro potencial en sectores de futuro al tiempo que apalancan nuestro desarrollo económico y social permitiendo además mejorar el producto interior bruto potencial de euskadi aquí se hace necesaria la inversión pública y una intensa colaboración público privada

en la movilidad sostenible en la ciberseguridad y salud y en el cuidado de las personas

que sumen a la estrategia global de euskadi por eso veremos por ejemplo

en cuanto a la estrategia naturclima en cuanto a la estrategia del cambio climático

o proyectos de desarrollo implantación de sistemas tecnológicos para una movilidad inteligente ecológica e integrada veremos seguramente proyectos del impulso a la cultura y su industria y

también veremos proyectos que se acogen a una movilidad segura sostenible y conectada

es el de las oportunidades de aceleración en ámbitos estratégicos

innovación y digitalización prevención de desastres naturales y aprendizaje a lo largo de la vida en el programa euskadi next como la gran apuesta de futuro y superación de la crisis

y definidos por el gobierno vasco como la creación de una agenda vasca de capacidades para una economía de los cuidados poniendo las bases para la profesionalización del sector de los cuidados también deben incorporarse proyectos de regeneración urbana integral

con intervenciones de carácter holístico que permitan revertir las condiciones de vulnerabilidad en perfecto partenariado con los ayuntamientos y con agentes privados en euskadi next tenemos que encontrar iniciativas de intermediación

y programas renove para la rehabilitación integral como una oportunidad también para la creación de empleo

público de vivienda en alquiler energético y conseguir un consumo energético casi nulo en el cien por ciento de los edificios en dos mil cincuenta y podremos ver planes también de electrificación renovable en el parque de viviendas sociales en alquiler

podremos ver cómo hay proyectos estratégicos municipales para la eficiencia energética de edificios en la apuesta por su lucha contra el cambio climático o de atracción del talento para asentar

en definitiva euskadi next debe ser la proyección de nuestra capacidad de superación

social económica y territorialmente tiene que ser un programa para dar oportunidades a la juventud y seguridad como decía en los cuidados a las personas mayores

no es un debate sobre el pasado es un debate de futuro sobre la euskadi en la que queremos vivir y los instrumentos para hacerla posible somos nosotros y nosotras mismas quienes debemos definir esa euskadi futura que necesita del alineamiento de todas las políticas y proyectos estratégicos desde los ayuntamientos

algo que los socialistas hemos planteado en el acuerdo de gobierno es la necesidad de la cogobernanza el alineamiento y la complementariedad de todas las políticas de todos los gobiernos en una misma dirección es una oportunidad y un ámbito tan importante como los fondos

tan importante como los fondos europeos debemos actuar con inteligencia los fondos son finitos y por eso hay que priorizar lo importante

y proyectos y componentes que afecten al mayor número de ámbitos posibles en base a la estrategia planteada por europa y por españa aquí no se puede jugar

que las reglas de juego no van a ser flexibles que hay que cumplir cronogramas que hay que cumplir hitos y por tanto hay que hacer frente a nuestra realidad institucional municipal conformada por pequeños y medianos municipios

hay que facilitarles el acceso a la financiación y por eso instamos al gobierno vasco a que de forma alineada con el trabajo que se va a desarrollar en el seno de la comisión interdepartamental

trabaje de forma coordinada con eudel para garantizar

que pueda atender proyectos y actuaciones en el ámbito municipal a través de líneas subvencionales que impacten en los componentes recogidos en dicho programa

con la movilidad sostenible y con la eficiencia energética así que con la participación de todos espero que el próximo veintinueve de diciembre el consejo de gobierno apruebe el euskadi next porque como decía mi portavoz eneko andueza

si hacemos esto bien si acertamos con los proyectos y no nos enredamos en disputas partidistas menores ganaremos todos ganará euskadi

fortalecida con empleos de calidad y socialmente cohesionada y yo me alegro de que hayamos podido tener

algunos motivos para plantear transacciones porque a nosotros si nos parecía importante el poder incorporar los principios de los que euskal herria bildu planteaba el estado emprendedor la mirada feminista no dañar el planeta un empleo de calidad entendíamos que eso podía aportar a más a más

resoluciones de esos criterios pero bueno siempre no viene mal el reiterarlos y es verdad no habíamos contemplado la cuestión de los proyectos transfronterizos el criterio de que podía sumar

con comunidades autónomas cercanas que también tienen posibilidades de presentar proyectos y que sumando

no ha sido posible pero bueno quizás en otra ocasión en otro momento quizás con otros proyectos se puedan llevar adelante estos criterios

de resoluciones porque más que hablar de resoluciones de proyectos en concreto

no daba tiempo como decía alguien no sé quién ustedes han presentado sesenta y seis pues seguramente todos hubiesemos presentado un listado y este no es el marco

que ustedes lo trajeran así pero bueno esa es una estrategia de cada uno y también quiero dejar de relieve que si la transacción que se hace entre euskal herria bildu y el elkarrekin podemos izquierda unida es una entiendo que es una que contempla

general no ha habido posibilidades de negociar más pues bueno en ese camino lamentablemente nos hemos unido los grupos de gobierno que no hemos podido

con ustedes habíamos ofrecido una transacción a tres porque también ustedes hablaban de la colaboración de comunidades autónomas y de la cuestión transfronteriza pero como no ha sido posible

tiene la palabra por el grupo nacionalistas vascos la señora berrojalbiz

yo confundida presentar las propuestas de resolución el debate de nuestras ideas correspondía a esta mañana y creo que todos los grupos hemos tenido la oportunidad de hacerlo largo y tendido no creo que

repetir nuestras argumentaciones aunque como tantas veces lo habéis repetido lo de la improvisación de la transferencia señor soto acabo de pedir al congreso de los diputados y al senado

de los partidos sobre los fondos europeos me dicen que no hay puede ser posible

ya se estaría ejecutando en madrid y que vuestra solicitud era pues un espejo de lo que ejecutaban ustedes como parte del gobierno en madrid

eta berriz diot otero jauna tiran la piedra y esconden la mano

porque se puede criticar sí pero sin maldad sin embarrar y sin desgastar

y no en lo que a ustedes les conviene como partido a todos y a todas nos iría mejor tampoco creo que me corresponde a mí aclarar

y no a este parlamento como poder legislativo nosotros debemos controlar al gobierno pero no asumir sus funciones ejecutivas euskadi next programak

eta ekonomia suspertzeko eta enplegua sustatzeko berpiztu programaren osagarri izango da el compromiso por el empleo y la reactivación económica

hacer lo que haga falta para mantener todo el empleo posible y recuperar todo el empleo perdido ya le he dicho esta mañana la estrategia está integrada en un proyecto global de país el desarrollo humano sostenible y contribuya al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible dos mil treinta de naciones unidas

para alinear y orientar los recursos y esfuerzos públicos y privados hacia la construcción de una europa ecológica digital y resiliente a través del crecimiento sostenible e integrador

euskadi comparte y asume estas orientaciones como base para la definición de su estrategia de crecimiento sostenible estableciendo una relación de los ejes de su estrategia y de los instrumentos europeos de recuperación de este modo el eje de reactivación económica

del programa react eu para la cohesión social y territorial a todo ello debemos unir

unos instrumentos que guiarán las políticas públicas en materias prioritarias como la innovación el empleo la educación o la salud el consejo de gobierno aprobó ayer la planificación estratégica para la legislatura

prosperidad personas planeta y autogobierno los planes estratégicos se refieren a cuestiones como la ciencia tecnología e innovación la seguridad pública el empleo

y la internacionalización también se aprobarán planes estratégicos de transición energética y cambio climático economía circular y bioeconomía educación vivienda regeneración urbana

justicia y políticas de euskera y cultura turismo y comercio por otra parte se aprobarán los planes que forman parte del programa marco para la reactivación económica y

además de todos estos planes estratégicos el gobierno vasco aprobará setenta y ocho planes y estrategias complementarias

ahora que nos digan que jugamos a la improvisación y que vamos tarde

ya que no nos debemos olvidar que los proyectos incluidos en euskadi next deben estar alineados con estrategias de nuestro país y a la vez responderán los criterios que marca la comisión para beneficiarse de los fondos extraordinarios para el ejercicio dos mil veintiséis y deberán responder a

también deben ser viables alineados con los ámbitos marcados por la unión europea y con los recursos suficientes para su sostenibilidad futura factibles desde un punto de vista técnico que su ejecución se complete antes de diciembre del dos mil veintiséis tal y como lo exige la comisión y que sean

por tanto una vez definido el planteamiento estratégico y el marco conceptual los proyectos se deben alinear con los criterios establecidos por la unión europea en términos de plazos hitos

muy realista en cuanto a cumplimientos de hitos ya que los fondos están condicionados a su ejecución anual los proyectos

en una mejor posición de salida que la del resto del mundo mejor punto de partida para la reactivación

porque preferimos mirar a otras regiones más innovadoras de europa pero en este momento

es necesario recordar estos datos la innovación industrial con la innovación de la construcción van a posibilidad una reactivación económica sostenible y justa eta aurrekoa esanda considerando esta estrategia y el marco normativo europeo hemos planteado nuestras propuestas de resolución

que recogen nuestras propuestas y que ojalá viendo el objetivo de las mismas podamos llegar a un amplio consenso

ejecutables en plazos que tengan capacidad de absorción si no los fondos se verán mermados la inversión pública debe apalancar o acelerar la inversión privada

europa ha puesto dos los siete ámbitos emblemáticos y las recomendaciones del semestre europeo

edo aurkeztu ditugun proposamenak gobernantzaren inguruan el para qué del feder y el mrr es muy similar y mejoraría claramente nuestra posición anticipos plazos todo encaja

por tanto habrá que pelear para que al menos respeten nuestro marco competencial y la que debe ser nuestra relación habitual de colaboración y gobernanza

hirugarrenik gure ebazpenen hirugarren ildoa haciendo un trabajo coordinado con eudel en beneficio de todos los ayuntamientos para que puedan verse beneficiados de los fondos capilarizándolos y lograr la transformación que queremos a través de los municipios

haciendo un trabajo coordinado con los sectores económicos y sociales como ya estamos haciendo hace meses atrás

eso sí sin que la carga administrativa sea un lastre por tanto proponiendo agilizar

hemeretzigarrena ebazpena y en esta línea nuestras propuestas

no somos ni inflexibles tampoco nosotros nos adaptamos a la realidad y necesidades de nuestra ciudadanía

uno es la sostenibilidad y qué hacemos con el planeta y ahí

las energías verdes y la modernización de nuestras estructuras hay

como nación de personas y tenemos que mejorarlos somos conscientes

y estamos preocupadas y ocupados por la competitividad de nuestras empresas asumo que ustedes también pero en el partido nacionalista vasco nos adaptamos y adaptaremos siempre

lideramos el país cuando la situación lo requiere os recuerdo hitos como la creación de emakunde

políticas serias vamos por delante eso sí acompañando siempre las necesidades

a nuestra sociedad trabajar y trabajar es una apuesta de país porque nosotros tenemos claro qué país queremos

necesaria apuesta por la eficiencia energética la puesta en marcha en dos mil veintiuno del programa

dirigida a entidades locales dotado con cien millónes de euros para la financiación en actuaciones municipales

beste adibide bat gehiago no quería terminar sin agradecer desde mi posición de ciudadana

el esfuerzo y trabajo del gobierno vasco y de todas las instituciones involucradas en este proyecto

sabemos que son tiempos difíciles pero con rigor esfuerzo colaboración y trabajo en equipo lo lograremos

tener una industria avanza y competitiva ser referente en europa tener políticas sociales que tenemos las apuestas por el empleo y la calidad del empleo entre otras muchas apuestas

y en una mejor posición de salida para la recuperación y eso es gracias al trabajo del gobierno vasco durante muchos y muchos años es momento de aunar fuerzas sin colaboración no avanzaremos queremos ser la euskadi mirando a europa y al mundo euskadi basque country

de las confrontaciones pasemos a la colaboración y al consenso porque euskadi se construye con estas bases y la sociedad se lo merece nosotros les daremos aunque sea tarde la bienvenida a aquellos grupos que se vengan a aunar a estas fuerzas

se debería haber demostrado en este debate con un tema tan relevante como los fondos que acelerarán la reconstrucción de euskadi

siempre estaremos dispuestos a colaborar en beneficio de euskadi auzolanerako eta lankidetzarako

terminado este turno amplio de palabras cabe la posibilidad de una réplica la señora martínez dice que no va a intervenir por el grupo mixto el señor berrogeita seigarrena zintaren amaiera berrogeita zazpigarrena zintar en hasiera de palabras cabe la posibilidad de una réplica la señora martínez

soto sí va a intervenir tiene la palabra por el grupo elkarrekin podemos

vamos a ver por partes en primer lugar señora

que usted ha puesto encima de la mesa seguramente que lo tendríamos ningún inconveniente en acordar

una de nuestras resoluciones hablamos de la apuesta por la digitalización de la administración y del uso de los fondos europeos en este sentido habla de parques residenciales

también habla de recuperación de zonas degradadas

hacemos constar esto con ciertas especificaciones sí que es cierto también en relación con la política de cuidados y con este eje que debería de vertebrar

necesariamente y en un porcentaje elevado el documento definitivo que se envíe

que podría haber acuerdo pero es que no ha habido espacio para el acuerdo este es el único espacio que ha habido hasta hoy el único y no hemos tenido constancia de las resoluciones

y que nosotros íbamos a hacer lo propio y como bien se ha dicho antes no hemos recibido las resoluciones hasta hoy se nos dijo que hasta hoy no íbamos a recibirlas ya me dirá usted cómo íbamos a poder alinear como usted ha dicho en tan poco espacio de tiempo

y nosotras y seguramente que en muchas de ellas estaríamos de acuerdo lo que

y esperar a que en este margen de tiempo muy breve que no sabemos si será posible

si ni siquiera es virtualmente posible alcanzar a día de hoy acuerdos que se reflejen en ese documento porque sinceramente pensamos que a día de hoy ese documento está cerrado está cerrado y que hoy hemos venido aquí bueno pues a verbalizar

esa es básicamente la conclusión que sacamos y que derivamos de todo el debate que se ha dado porque la moción se aprobó en este parlamento hablaba de un modelo de participación colaborativa

una comisión la semana pasada ese es el modelo de participación colaborativa

parece ser que lo que nosotros hemos propuesto aquí no es algo que el gobierno de españa hace es que el gobierno de españa tiene un consejo consultivo

de hecho a día de hoy están cifrados la cantidad de proyectos que se han presentado en diferentes ministerios en relación

una comisión interdepartamental es decir los espacios copados por los partidos que sostienen al gobierno y punto

al seno del gobierno de españa esto es se asemeja a aquel programa y fíjense que esto es un elemento muy serio lo que estamos hablando hoy pero esto se asemeja al programa aquel de next en el que bueno se sucedía gente un programa bastante por cierto detestable en el que se sucedía gente y

decías next pues aquí con las resoluciones es exactamente lo mismo pero una tras otra

a todas las propuestas de los partidos de la oposición en bloque además

que propone el gobierno vasco o por lo menos los partidos que sustentan al gobierno vasco en relación con la participación de los grupos de la oposición un next sucesivo entonces a nosotros sinceramente y suena muy duro decirlo

pero nos parece seriamente una pantomima una pantomima la moción que se aprobó

entre la sociedad civil empresarial y los grupos políticos aquí presentes primero porque no sabemos cuál ha sido el modelo de participación de la sociedad civil empresarial y desde luego

políticos presentes sí la conocemos ninguna ninguna todo lo que ha sido a instancia de la oposición y disculpe

a los grupos que sostienen al gobierno vasco y también al propio gobierno vasco y en este sentido decirle o decirles como he concluido en mi intervención inicial esperamos que en el margen que existe hasta el veintinueve de diciembre tengamos visos de poder encontrarnos en algún punto y podamos llegar a acuerdos en cuestiones que por lo que se ha verbalizado aquí en algunas de ellas seguro que habría opciones de acuerdo pero tienen que existir esos espacios y también esa metodología que se ha hablaba antes

una infinidad de proyectos como seguramente presentaríamos todos los partidos o todos los grupos parlamentos aquí representados es complicado para ello es verdad que hace falta una metodología

ese fue el compromiso que se adquirió aquí en el seno del parlamento vasco

eskerrik asko gracias señor soto por el grupo

bueno se va acabando el día yo no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer al pnv haber traído a euskadi la ecología el feminismo los derechos

un amplio diálogo político y ustedes lo han traducido como sobre políticas es verdad que el término policy en inglés es un término ambivalente y puede dar lugar a interpretaciones

no haga el ejercicio de terminar la frase que está leyendo porque esa misma frase lo que decía

incluyendo a todas las partes interesadas importantes yo lo que le digo les digo en todo el proceso es que este parlamento es una partida interesada importante euskal herria bildu es una parte interesada importante con su representación de doscientos cincuenta mil personas eso es lo que les estamos diciendo ese es el amplio diálogo

es mío el listado es mío los proyectos son míos ezta ikusi ere ezta eztabaidatu ere

gracias señor otero por el grupo vasco popular ciudadanos no van a intervenir por el grupo

no hemos pretendido hoy hacer de este debate un concurso de ideas o un concurso de proyectos señor soto que pudieran quedar muy bien en una foto pero que no tuviesen ningún estudio tasado riguroso para hacerlos viables porque se hubiesen quedado además en el tintero

que aprobamos en este pleno porque el punto tres no dice lo que usted ha comentado en esta

no habla de los grupos políticos ni de los grupos parlamentarios revise punto tres de la enmienda que se aprobó miren nuestras propuestas de resolución marcan

con la finalidad de que esos fondos europeos nos permitan dar pasos sobre la euskadi en la que queremos vivir como izquierda vasca responsable los socialistas vascos queremos que este pleno proyecte a la ciudadanía que hay un rumbo definido para aprovechar la gran ventana de oportunidad que se nos abre con las grandes transiciones que ya están en marcha la digital la ecológica y la demográfica

con un doble programa por un lado nuestra hoja de ruta que estaba alineada con los objetivos de la agenda

el de las bases para la reconstrucción social y económica de euskadi sustentadas en tres principios garantizar la salud de la ciudadanía la reactivación económica y del empleo y el no dejar a nadie atrás y en su literalidad

para atender lo urgente y prácticamente en su integridad el resto del programa ha sido recogido como guía para el futuro de ahí la importancia para los socialistas vascos de basar euskadi next en el programa de gobierno

hemos planteado en este debate las orientaciones y las estrategias más oportunas para incardinar

primero del programa de gobierno entre los ciento cincuenta compromisos que contiene cuando la iniciativa uno propone elaborar coordinar e impulsar un programa marco para la reactivación económica y el empleo de carácter interdepartamental e interinstitucional

y estará alineado con la agenda dos mil treinta y los objetivos de desarrollo sostenible de naciones unidas así como con las prioridades de los programas europeos sure y next generation por lo tanto

es que el gobierno vasco tiene trazada la estrategia de resiliencia y de las transformaciones necesarias en euskadi para la recuperación económica y del empleo

de políticas de impulso de la recuperación están también trabajándose y estructurándose para no perder ni una sola oportunidad económica de los fondos europeos tenemos hoja de ruta para salir adelante cambiando euskadi para mejor

avanzado un territorio innovador y que además salga de la crisis en una buena posición hay estabilidad institucional y disposición también para amplios consensos

de transformar euskadi podrá haber estrategias hoy el debate señor soto el debate plenario no lo hemos traído los socialistas lo ha traído euskal herria bildu
a ellos el hecho de que no hayan salido propuestas gracias señora corcuera

tiene la palabra por el grupo nacionalistas vascos la señora berrojalbiz

tenemos un primer hito el día veintinueve de este mes pero luego quedan muchos meses por delante

y sería mejor hacerlo desde la colaboración porque ganaremos todos y todas esta es una cuestión de país nos jugamos mucho en ella pero han de saber que todos los proyectos todos los programas que sean sometidos a evaluación no responden a los criterios que este gobierno decide responden a los criterios que nos ha marcado europa y que como decía el sailburu

muy escrupulosos y muy exigentes la selección por tanto no quedará supeditada a los deseos del gobierno

hablamos de mucho dinero y hablamos de aprovecharlo bien para seguir transformando nuestras estructuras

sabemos que su gestión será complicada y tenemos que afinar bien sabemos que aún faltan muchas respuestas y que el gobierno español deberá detallar y aclarar muchas cuestiones y en ese trabajo

está haciendo todos los esfuerzos posibles para que llegue cuanta más ayuda o mejor espero que en esta cuestión no haya ni una duda porque sería tremendamente injusto

pero sí sabemos que se está trabajando duro para sacar el máximo provecho y para que euskadi pueda apuntalar los cambios y las transformaciones ya iniciadas hacia una euskadi más moderna más competitiva más digital y verde una sociedad solidaria y que piense en quien peor lo está pasando

y por eso trabajamos lo hemos hecho sin estos recursos adicionales que nos van a llegar y que cuando lleguen contribuirán y mucho a acelerar todas estas transformaciones

ojalá entendamos que la unión siempre será mejor que la desunión y lo haremos con el veto de polonia y hungría lo hemos visto en la ue

se han superado estos vetos con la palabra y el debate me gustaría que aquí también nos acerquemos y no nos alejemos beste barik eskerrik asko

se ha concluido el turno de intervenciones y ahora tenemos que organizar las votaciones habíamos hecho

porque hay ciento dieciocho resoluciones y queríamos simplificar en la medida de lo posible parece que ese cuadro hay que trastocarlo un poquito

se haga esa corrección aproximadamente cinco o diez minutos lo que vamos a hacer es suspender ahora y cuando vayamos a proceder a la reanudación